sí gracias presidenta buenas tardes a todos tal como

en la última ocasión que presenté una iniciativa para reclamar justicia para las víctimas de los crímenes cometidos por eta no resueltos que fue sino recuerdo mal el día veintiocho de junio del año pasado nos encontramos

político caracterizado por la intención de no pocos agentes políticos y sociales de tratar de situar en el centro del debate político a los presos de eta reivindicaciones presentarlos incluso como víctimas y marginar a su vez a las víctimas del terrorismo y sus legitimas reivindicaciones que nosotros

pretende hacernos creer que el problema actual del país vasco situación de los presos terroristas obviando voluntaria y cínicamente que todos ellos cumplen condena por delitos perfectamente tipificados en el código penal el problema no es tanto ese como cuando los partidos democráticos se ven abducidos por este disparate y terminan asumiendo que los presos de eta son un problema para los demócratas y se pasan todo el día

los trescientos sesenta y cinco días del año hablando de presos de eta hablando de la política penitenciaria o hablando y planteando la necesidad de modificar

de ahí la pretensión permanente de algunos grupos de esta cámara por poner en marcha esa

que volver a poner en el centro del debate a los presos de eta el último informe del observatorio contra la impunidad habla de más de trescientos crimines cometidos por la banda terrorista que a día de hoy siguen sin estar resueltos ante esta realidad

y tomar medidas y en nuestra opinión no se han tomado las medidas necesarias durante

por tanto el gobierno de españa y el gobierno vasco deberían hacer todo lo posible y a eso les instamos para recordar permanentemente este hecho al conjunto de la ciudadanía

puedan ser resueltos cuanto antes pensamos que es un asunto prioritario para los demócratas no se ha hecho ni mucho menos todo lo que debería haberse hecho

jorge martínez reverte en un articulo publicado hace unos meses en el país antes de preocuparnos por asesinos que no se arrepienten hay que pedirles que cuenten todo lo que saben en este sentido es curioso que no hayamos escuchado nunca una reflexión sobre este hecho al menos con toda la contundencia necesaria

mientras sí que insisten insistían siguen insistiendo en el acercamiento de los presos de eta o en el cambio de la política penitenciaria nos parece un grave

y de las administraciones de los poderes públicos recordar no solo que eta debe disolverse

sino recordar también siguen estando pendientes de resolver nada menos que

todavía pendientes a día de hoy de resolverse y obviamente tanto los representantes políticos como el conjunto de los poderes públicos de los gobiernos deben de hacer todo lo posible y de manera en nuestra opinión absolutamente prioritaria

cuanto antes no puede ser que los partidos políticos estén más pendientes de los victimarios que de los damnificados por la organización

no puede ser que los partidos políticos presten más atención a los presos terroristas que a las legitimas reivindicaciones de las víctimas del terrorismo nosotros presentamos en su momento una interpelación y presentamos la correspondiente moción durante la pasada legislatura

porque en nuestra opinión y a los hechos me remito poco o nada se ha avanzado asunto la fundación de víctimas del terrorismo sostenía hace unos meses que más de un cuarenta por ciento de los asesinatos cometidos por eta han salido

desde mil novecientos setenta y ocho existen a día de hoy trescientos veintiséis víctimas mortales sin sentencia de autor material cuatro de cada diez

están sin resolver a día de hoy como decía en ese artículo

muchos de los que defienden con tanto apresuramiento la reinserción de los presos olvidan que hay aún trescientos veintiséis asesinatos de eta pendientes de ser resueltos

a sus familiares esta es la realidad de los hechos que nosotros hemos querido volver a poner encima de la mesa y traer a esta cámara por lo tanto menos hablar de presos

y más ocuparse de las víctimas menos ponencias

y más propuestas para hacer justicia y más propuestas para las víctimas aunque no está reflejado expresamente en esta

es que el gobierno de españa en el desarrollo y la aplicación de la política penitenciaria que aplique a los presos condenados por terrorismo

debería condicionar el acceso a planes de reinserción o la obtención de beneficios penitenciarios al cumplimiento

cosa que no está haciendo desvinculación definitiva pública de la banda petición de perdón

asunción de la responsabilidad civil derivada de las acciones por las que fue condenado y colaboración con las autoridades y la justicia para la resolución de los delitos terroristas no resueltos queremos upyd quiere que la colaboración con la justicia sea exigible

que soliciten acercamiento o cambio de grado o cualquier ventaja del régimen penitenciario somos partidarios de aplicar la ley penitenciaria de manera

que lo demuestre y no hay mejor forma de demostrar que un preso está arrepentido que decir que quiere cumplir la pena pero no solo eso

lo cierto es que los presos de eta no están colaborando con la justicia sino más bien todo lo contrario hay una pretensión claramente visible de acabar poco a poco con la voz de las víctimas y de quienes les apoyan para ir solventando el asunto poco a poco hay quienes de un modo u otro piden a las víctimas que guarden

no estamos dispuestos a ello de ahí la iniciativa que planteamos y de ahí también la enmienda transaccional que ya les anuncio hemos firmado con el grupo popular

que consta de cuatro puntos los tres primeros son básicamente los que nosotros habíamos planteado y hemos modificado para mejorarlo entiendo yo el último de los puntos ese último punto lo que propone es que este parlamento inste al fiscal general del estado escrupulosamente su compromiso con las víctimas del terrorismo expresado en la carta remitida a las víctimas del terrorismo en concreto a covite en concreto a consuelo

el fiscal en esa carta en respuesta a una carta de consuelo ordóñez era que

han sido y serán objeto de atención especial por parte de esta institución desde donde se impulsarán las actuaciones que sean precisas para que tales hechos tengan la respuesta judicial correspondiente nosotros esperamos que eso sea así y a nosotros nos gustaría que todos los demócratas presentes en esta cámara

iniciativa una iniciativa que es de justicia que es perfectamente razonable y que quiere volver a recordar que existen más de trescientos crímenes cometidos por eta pendientes

han presentado una serie de enmiendas en nuestra opinión la enmienda socialista es excesivamente y viene a proponer que el parlamento vasco

en sus esfuerzos para esclarecer los atentados de eta que aún no han podido ser resuelto nosotros pensamos que el gobierno de españa el gobierno vasco y el poder judicial puede y debe hacer mucho más de hecho ya digo que todavía existen

de resolución y en su segundo punto insiste en defender una política penitenciaria que permita la recuperación para la democracia de los penados nosotros queremos poner encima de la mesa hoy la necesidad de que haya una política penitenciaria

y de eso no se dice nada al menos expresamente y en relación a la enmienda del grupo nacionalistas vascos olvida absolutamente la existencia

sin resolución y se centra exclusivamente en volver a defender la reinserción de los presos de eta por lo tanto la única posibilidad que hemos tenido es acordar esa enmienda de transacción

no quiero emplear mucho tiempo en un debate que como ya ha dicho el señor maneiro fue con el que terminamos

y es con el que el señor maneiro quiere que empecemos también esta legislatura un debate sobre una propuesta que además de ser reiterativa

a la causa que dice defender todo lo contrario creemos que la perjudica notablemente porque todo lo que se hace desde el partidismo estrecho

de las libertades y del fin de eta que quiero pensar que es lo que usted persigue también en cualquier caso y para que no haya lugar a dudas sobre nuestra posición los socialistas vascos hemos presentado una enmienda a la totalidad eque por cierto es exactamente la misma que aprobamos

y que pensamos que sigue siendo perfecta y absolutamente válida en este momento

con las victimas del terrorismo y por eso como hemos hecho siempre por cierto en las más variadas circunstancias expresamos nuestro respaldo al gobierno vasco al gobierno de españa

en sus esfuerzos por esclarecer los atentados de eta y nos ratificamos también en el principio constitucional ypor cierto señor maneiro constitucional

la justicia y la reinserción del penado los dos en igualdad de condiciones los dos usted se olvida del segundo y por eso instamos igualmente al gobierno de españa a la asunción de una política penitenciaria que con todo el rigor necesario pero también con toda la inteligencia necesaria

de los penados recuperación que es verdad que se debe hacer sobre la base de la decisión individual de cada recluso

la ilegitimidad del uso de la violencia de asumir su responsabilidad personal dentro del marco legal y nuestra propuesta y esa es la gran diferencia de nuestra propuesta con la suya

parte de la confianza absoluta en el funcionamiento del estado de derecho del gobierno de españa del gobierno vasco del poder judicial en el pleno convencimiento de que están haciendo todo lo que es necesario hacer y por cierto la suya

más insultante todavía cuando ha sido precisamente esa actuación del gobierno de españa del gobierno vasco y del poder judicial

desista de su actividad criminal y por eso tengo que decirle que nos parece bastante insultante lo que usted pretende con ese debate

sobre la forma de actuar de los gobiernos competentes y legítimos en materia de lucha contra el terrorismo y de paso hacer creer que las instituciones no van respetar los derechos de las víctimas

para favorecer a los victimarios y renegar de las victimas y eso sabe usted señor maneiro que es absolutamente falso y que no se puede pretender

la sombra de la insidia y del descrédito sobre todos los demás que no piensan como usted eskerrik asko pastor jauna euskal talde popularraren ordezkaria den

muchas gracias señora presidenta buenas tardes señoras y señores parlamentarios

eta y sus miembros en su macabra labor de masacre sobre la sociedad vasca durante los últimos años

más de trescientos no resueltos un número global de doscientos setenta procedimientos penales que están aún sin identificar quienes han sido responsables

de todos estos crímenes eso nunca nos va a poder

por muchas veces que traiga este debate a esta cámara

indiferentes esta cuestión y tenemos que decir y lo hemos dicho lo que planteamos en esta iniciativa yo creo que en este sentido lo que tenemos que decir

todos los pasos todas las actuaciones todas las investigaciones para aclarar para desenmascarar los crímenes y los asesinatos de eta

y es una exigencia para nosotros moral de una sociedad democrática y es una exigencia legal en consonancia con lo planteado por la audiencia nacional por su fiscalía y sobre todo por las exigencias de la fundación de víctimas del terrorismo y por el conjunto de colectivos de víctimas

no deben de cesar la actuación de los poderes del estado para el esclarecimiento y la identificación

se han producido sin que se identifique judicialmente al responsable o responsables y esa impunidad es inasumible por una sociedad democrática sin que reaccione

cuantas veces haga falta fue una buena noticia para las víctimas que el fiscal general del estado el señor torres dulce anunciara a covite que desde la fiscalía general se impulsarán las actuaciones que sean precisas para que los asesinatos de la banda terrorista eta que aún no han sido resueltos

la respuesta judicial correspondiente y también sus palabras serán objeto de atención especial esta comunicación de cuatro de diciembre de dos mil doce

se complementa también de una manera positiva con las declaraciones y el posicionamiento que el fiscal jefe de la audiencia nacional realizó en san sebastián el pasado veintitrés de noviembre es de agradecer desde luego para el estado de derecho

se manifestó el fiscal jefe de la audiencia nacional javier zaragoza cuando dijo

evitar la prescripción de los atentados terroristas también dijo el fiscal

de los asesinatos de eta no resueltos y prescritos hay que trabajar

y esto es importante y ofrecer la verdad de lo que ocurrió a las víctimas del terrorismo no solamente justicia justicia y verdad las dos cuestiones van unidas eso es importante también

se ha puesto a disposición de las víctimas y les ha recordado que está trabajando en la revisión de los asesinatos cometidos por eta desde

así ha nombrado a dos fiscales para que se dediquen a revisar año a año

y dos mil uno con el fin de que se reabran y eludir la prescripción de la misma forma que distará a la reapertura de los anteriores a esas fechas

es un planteamiento no solo profesional es un planteamiento ético y moral de exigencia en esta sociedad

que según el informe elaborado a instancias de la fundación de víctimas del terrorismo se estableció en trescientos cuarenta y nueve el número de atentados sin resolver

señaló que en algunos se han logrado avances pero una parte importante son de finales de los años setenta y principios de los ochenta por lo que su reapertura difícilmente podría

sí a esclarecer la verdad y a eso también nosotros tenemos que ayudar los gobiernos también tienen que ayudar a que esa verdad prevalezca

del terrorismo sustentado en la impunidad y en la justicia

va también y nuestras instancias en esa iniciativa en ese sentido habrá justicia que no es ni más ni menos que la aplicación de la ley penal contra sus consecuencias a aquellos que han cometido delitos graves

son estas declaraciones desde nuestro punto de vista importantes

que hemos firmado es oportuna ya que estas declaraciones son del mes pasado o sea que conectan también no solamente con el debate que tuvimos la legislatura anterior sino vuelven a estar en boga vuelven a ser importantes y presentes y quiere decir que los jueces

general del estado como el fiscal jefe de la audiencia nacional han anunciado

los jueces tendrán que seguir pronunciándose tras el trabajo de las fiscalías y también las policías la ertzaintza los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado tcomo no podría ser de otra manera pero bueno es bueno repetirlo y tenerlo siempre presentec deberán

que recabar datos sobre los crímenes de eta en cualquier caso bien hemos presentado esa enmienda de transacción con el grupo upyd

ya ha dicho lo básico de la enmienda de transacción que tienen todos ustedes

es una declaración de principios entendemos nosotros que el parlamento vasco defienda la necesidad de resolver todos y cada uno de los crímenes cometidos

puedan recibir la justicia que aún sin duda se merecen es un principio

y supongo que nadie se opondrá a esa

algún problema con alguno de los otros puntos que pida una votación separada yo creo que no tendríamos ningún problema ni el señor maneiro ni yo en asumir esa votación en relación con las enmiendas

presentadas nosotros desde luego también compartimos

buena normal es decir que nosotros también compartimos nosotros sentimos el hecho de que el grupo enmendante en este caso ustedes

en cualquier caso nosotros su enmienda pues también la compartimos nos parece correcta y la podríamos votar a favor en cualquier caso y en relación con la enmienda que presenta el partido nacionalista vasco debemos de decir que en el grupo nacionalista vasco se sigue moviendo

obsesivo planteamiento sobre la política penitenciaria permanentemente

en este tema no estamos hablando de la política penitenciaria directamente estamos hablando de otras cuestiones

desvían la atención de lo que plantea esta proposición no de ley una especie

se refiere al planteamiento de esta iniciativa yo creo que el partido nacionalista vasco se escapa de una declaración concreta sobre los crímenes sin esclarecer y evita lamentablemente que se inste también al gobierno vasco nosotros lo hacemos también al gobierno

en la labor de esclarecer los crímenes de eta de los que no se ha identificado aún a sus responsables por lo menos yo estoy seguro de que lo hará de que el gobierno vasco

deberá actuar pero nos hubiera gustado un planteamiento más propositivo

clara que no tiene que interpretarse de ninguna otra manera es decir nuestro grupo

lamentamos la posición de otros grupos bueno todavía tienen que explicar aquí su actitud

réplica pero sí que voy a contestar algunas cosas el señor pastor dice que es una propuesta reiterativa bueno

recordaran el pasado día veintiocho de junio han pasado unos cuantos meses no se han producido prácticamente avances en la materia o muy limitados y nuestra obligación es volver a traer aquí

detalle de que hay más de trescientos crímenes cometidos por eta pendientes de resolución esto

esto es una reivindicación de miles de ciudadanos de las víctimas del terrorismo

cualquier ciudadano decente que lo que pide

partidista no entiendo yo que defender la justicia sea

tiene la voluntad o el doble objetivo de lograr la reinserción de los presos

y yo le recuerdo que el asunto es que los presos de eta no quieren colaborar con la justicia es decir saben saben cosas pero no las quieren contar

avanzar se puedan dar avances en lo que es la resolución de estos crímenes pendientes y mientras mantienen esa actitud insultante

eso sí piden beneficios penitenciarios o poder acceder a determinados planes de reinserción y nosotros lo que podemos poner encima de la mesa es que los presos de eta siguen sin querer colaborar con la justicia y es lo que también está ahí reflejado

transaccional usted tiene el pleno convencimiento de que el gobierno vasco el gobierno de españa y el poder judicial están prácticamente haciendo todo lo que pueden nuestra opinión es la contraria nosotros pensamos que tanto el gobierno vasco como el gobierno de españa como el poder judicial pueden hacer mucho más porque

resolver por lo tanto algo más habrá que hacer y eso es lo que nosotros proponemos en esa enmienda transaccional insisto

todavía no se han resuelto esta es la realidad de los hechos y por lo tanto no nos podemos sentir conformistas con la realidad de los hechos y por eso volvemos a traer este asunto al debate nuestra opinión

ni el poder judicial a hecho en este asunto todo lo que ha podido no puede ser que sea un colectivo de víctimas del terrorismo o personas individuales

políticos el propio poder judicial el que dé pasos para aclarar estos crímenes y no se han dado todos los pasos suficientes esa es nuestra opinión y en eso nos mantenemos señor egibar ustedes quieren o no quieren esclarecer los crímenes cometidos esa es la pregunta que nosotros queremos hacerles a ustedes pues si están de acuerdo hagan el favor de votar a favor de esta iniciativa que hemos planteado que únicamente plantea eso

estos crímenes pendientes no es cuestión

de esa rotonda de la que usted hablaba sino de que se haga justicia y tampoco queremos ya le digo nosotros no queremos ir a ningún sitio en concreto

las mismas ideas que hemos defendido siempre nosotros queremos mantenernos en nuestras posiciones democráticas y por lo tanto no hay ningún sitio especial al que ir

el resto de partidos políticos o que otros partidos políticos asumen no hay ningún lugar al que ir más que mantenernos en nuestras posiciones democráticas y de exigencias

en demócratas y por lo tanto tampoco pensamos que volver a reclamar justicia sea

otra vez encima de la mesa por lo tanto si quieren justicia pueden votar a favor de esta iniciativa y otra vez me da usted la sensación de que usted gasta mucha más energía en defender

que en este tema en concreto es ciertamente curioso que tenga que ser otra vez upyd

volver a poner encima de la mesa un asunto que es de extraordinaria importancia es un hecho ciertamente curioso a mí me sorprende y me sorprende todavía mucho más que esta

aprobada me parece que esa actitud del resto de partidos políticos dice muy poco

me parece ciertamente lamentable que haya partidos políticos que haya parlamentarios que no digan que sí hay que esclarecer los crímenes cometidos por eta y que lo digan claramente y que no se pongan a hablar de política penitenciaria de reinserción o de ponencias estamos hablando hoy aquí de lo que estamos hablando un tema de plena actualidad un tema de plena actualidad que lo debatimos el día veintiocho de junio pasado

que aguantar bastantes insultos en fin el debate de hoy ha sido más calmado me alegro

es que entre todos entre todos los demócratas podamos dar pasos
para que se haga justicia y se esclarezcan esos crímenes pendientes de resolver nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna jarraian euskal sozialistak

mire señor maneiro nosotros también queremos que se aplique la justicia

pero no vamos a votar su proposición no establezca usted esa especie de axioma de blanco o negro o apoyamos lo que usted dice o estamos en contra

de la desconfianza hacia los gobiernos y hacia el estado de derecho porque claro decir lo que usted dice es como decir no hacen ustedes lo que tienen que hacer no están trabajando como deben de trabajar están dejando que los crímenes de eta queden impunes y no es verdad

salvo que se quiera crear intencionadamente un clima de desconfianza total hacia las instituciones hacia el gobierno de españa hacia el gobierno vasco hacia la justicia y hacia la policía también señor maneiro o le cabe a usted alguna duda

aquellos terroristas que primero se encuentran se detienen y contra los que hay pruebas fehacientes para juzgarlos

luego se hace todo lo que se puede hacer y con todo el entusiasmo del mundo y lo contrario y lo contrario

como usted dice y como usted lo expresa todos los demás estaríamos haciendo el papel de tonto útil

de apoyar los victimarios y de dejar abandonadas a las víctimas y no es verdad señor maneiro no es verdad para hacer que el estado de derecho sea eficaz hay que respaldarlo y no sembrar dudas sobre su comportamiento y sobre su actuación porque le vuelvo a decir ha sido el estado de derecho

deje las armas y haya desaparecido y haya anunciado el cese definitivo de su actividad

uno se encuentra con situaciones pintorescas pintoresca me parece señor egibar la enmienda que ustedes han presentado que me parece muy bien que se haga una reflexión

el cuidado del mundo sobre la política penitenciaria hombre alguna reflexión reflexión sobre el tema de las víctimas y de los delitos cometidos

independientemente de que se habla de la política penitenciaria también hablamos nosotros

absolutamente esa situación aunque esquivarla del todo hacen los señores de bildu que ni siquiera intervienen para que no se les note mucho

a ver si el viento me pasa sin tocarme y disimulamos todo lo que podamos

con más tranquilidad con más sentido común sin hacer ninguna actuación histriónica y teatral para parecer que uno es más machoman que nadie en el tema de la lucha contra eta porque en fin si alguien tiene una experiencia muy acreditada de la lucha contra eta y de sufrir por eso

entonces no le vamos a permitir que usted nos quiera dar lecciones en ese sentido

con un cariz o con otro con una retórica o con otra lo que hay que hacer no es exigirle al gobierno y sembrar desconfianza lo que hacer es apoyarle al gobierno de españa

a los jueces y a la policía para que hagan como están haciendo lo que tienen que hacer y después vuelvo a decirle aplicar la política penitenciaria con el espíritu que tiene la propia ley

rigurosa por supuesto con ánimo de reinserción también exactamente igual con la misma intensidad desde el punto de vista individual por supuesto

pero no se olvide que el código penal español y la ley penitenciaria tiene un objetivo fundamental que es la reinserción del penado

que todos ponemos como ejemplo de lo que hay que hacer también hablaba de que hay que buscar la reinserción de los penados penados por distintos delitos en este caso muy graves de terrorismo

por supuesto pero eso tiene que estar también en el discurso de todos eskerrik asko pastor jauna euskal talde popularraren ordezkaria den

brevemente ya he dicho antes en mi intervención cuáles eran las instituciones y he hecho referencia a dos importantes instituciones del estado en este sentido

no voy a repetir lo que yo ya he planteado aquí pero yo creo que eso sirve de referencia en relación con lo que se ha hecho con lo que se hace y con lo que se va a hacer

es seguir instando es seguir impulsando es seguir fortaleciendo esa cuestión en relación con el esclarecimiento de los crímenes

de las declaraciones y los pronunciamientos de estas instituciones del mes pasado

en esta cuestión y en estos temas en relación con salirse del debate principal en irse por las ramas

también lo era con la enmienda que presentó y que ha presentado y que está viva en relación con la ponencia de paz y convivencia pero ahora también

obsesiva cuestión de la política penitenciaria y aquí no estábamos hablando de esto presente usted

una proposición no de ley sobre esta cuestión por cierto le recordaré y le recordaremos ese debate pero bueno podremos hablar de la cuestión que la política penitenciaria es competencia del gobierno de españa en relación con estas cuestiones pero efectivamente usted podrá hablar de ello

la ponencia de paz y convivencia pero en esta cuestión nos habíamos centrado en otro debate que supongo que usted habrá querido

al final no instar al gobierno vasco en esta cuestión

la justicia en lo que es el esclarecimiento de los crímenes de eta señor egibar yo le voy a decir bien claro nuestra posición no es dar vueltas a una rotonda

la proposición no de ley y nuestras actuaciones y nuestras declaraciones son claras yo creo que nosotros propiciamos más

de aceleración para entrar en la autopista en la búsqueda de la justicia en la búsqueda de la verdad y en la búsqueda de la no impunidad de los crímenes de eta

de aceleración y ustedes no sé si en una rotonda es posible que ustedes sean los que están en una rotonda a veces aunque con discursos aparentemente cambiantes pero

yo creo que a veces señor egibar ustedes están en un túnel en el que

en el que solo ven los fantasmas de la oscuridad en las que hoy a ustedes también

eso se lo digo sinceramente creo que es así en relación con estos temas y yo creo que están un poco más ustedes

yo también le agradezco que me recuerde algo

algo ha cambiado está claro nos afecta directamente y no le voy a recordar qué es pero le vuelvo a decir también y eso también será una cosa que lo digamos siempre porque yo creo que es una referencia importante que tenemos que tener siempre relación

que dejar de matar no tiene precio político y señor egibar no es venganza

al esperanto peninsular no impedir ni la clarificación de la responsabilidad que hay detrás de cada vulneración de derechos humanos ni la reparación que merece

lo que se quiere decir ustedes sabrán exactamente cómo interpretar estas palabras pero eso está claro nadie creo que haya dado orden de que se pare ninguna investigación que yo sepa o que no se celebre ningún juicio o que no se ejecute una pena o tiene usted alguna prueba

sin embargo yo sí creo que están girando en esa rotonda porque sí hay cuestiones

para que podamos avanzar y podían haber traído ustedes por ejemplo

incluso el artículo tres de los estatutos de sortu

para mí esto sí es relevante y lo voy a leer

desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos cualquiera que sea su origen y naturaleza rechazo

en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas desde esta declaración de carácter general

rechazo firme e inequívoco de todo acto de violencia y terrorismo y de sus autores rechazo de las diferentes formas de manifestación de la violencia

tal y como legislativamente han sido definidas en los diferentes apartados del artículo nueve de la ley orgánica de partidos políticos cuyos contenidos literales se dan por reproducidos e integrados en esta declaración

rechazo de quienes fomenten amparen o legitimen los actos de terrorismo oponiéndose de manera clara y expresa a cualquier justificación conceptual y cobertura ideológica de los mismos

y los instrumentos políticos que han sido ilegalizados por razón de esa connivencia así como con cualquier manifestación del fenómeno terrorista para la garantía de tales

está orientada a impedir la realización de actividades que la conviertan en instrumento de continuación o sustitución orgánica o funcional de los partidos políticos ilegalizados y disueltos en virtud de la sentencia de la sala especial del artículo sesenta y uno del tribunal supremo

no se trata de la reconstitución o refundación de organizaciones ilegalizadas sino de materializar una nítida separación y una indubitada ruptura respecto de ella yo me pregunto a los efectos de sin poner ni un pero

me refiero a la izquierda abertzale a la presente aquí suscribiendo entiendo que todos estos conceptos el criterio general y los específicos yo pregunto un preso puede ser de sortu

o conceptualmente porque si para hacer política uno personal u orgánicamente se acoge a semejantes

dentro de la misma legalidad podrá hacer el mismo recorrido

eso es salir de la rotonda porque eta tampoco puede diferir ty hablando de política

a todos y cada uno de los presos tendrá que adoptar alguna decisión orgánica estructural más allá de incorporarse a un proceso de disolución como organización de eso estamos hablando también de eso

la adecuación de esa política penitenciaria debe articularse de modo que no impida ni la clarificación de la responsabilidad que hay detrás de cada vulneración de derechos humanos ni la reparación que merece

que como el alejamiento se corresponden con estándares de excepcionalidad asimismo deberán aplicarse los beneficios penitenciarios ordinarios que legalmente corresponden a todas las presas y presos esa es nuestra posición

por lo menos marcamos no nos confundimos porque uno cuando se adentra en una rotonda si no

puede dar una vuelta para no terminar

hay que salir y el partido nacionalista propone salidas de esa rotonda eskerrik asko egibar jauna eztabaida

eskerrik asko mahaiburu andrea buenas tardes señorías buenas tardes lehendakari

efectivamente hoy vamos a debatir una proposición no de ley cuya parte tanto expositiva como dispositiva es clara y

presentado desde el grupo socialista para defender un derecho fundamental

no es más ni menos el derecho fundamental de toda la ciudadanía al acceso a la justicia la verdad es que no es momento de andarse por las ramas la ley de tasas judiciales del gobierno del partido popular no es solamente una de las leyes

inconstitucional porque vulnera de manera frontal

en condiciones de igualdad al consagrar una justicia para ricos

y así de triste la verdad es que nos llenamos mucho la boca pero en qué parte del camino nos hemos olvidado de todas esas cosas de todos esos principios con los que tanto por los que tanto hemos luchado esos principios de libertad de igualdad de justicia

señorías de limitar el acceso a los servicios esenciales como la justicia por motivos económicos tenemos hasta una frase hecha que va a pasar a los inefables

de citas hemos pasado de la tutela judicial efectiva a la tutela judicial en efectivo y no lo podemos permitir no recuerdo señorías hasta la fecha una ley que haya suscitado tanta oposición y rechazo en todos los sectores sociales asociaciones de usuarios

en todos en todos los ciudadanos de este país incluidos los que votan al partido popular es difícil comprender cómo un ministro de justicia se salta a la torera y con la más

de la oposición de los abogados y sus colegios de todas las asociaciones de jueces fiscales y secretarios de todos los operadores jurídicos de todo el mundo señorías quede claro que el tasazo y el tajazo que también se le ha dado en llamar

la posibilidad de reclamar y exigir justicia esa justificación señorías de que la ley mejorará el funcionamiento de la justicia en nuestro país y que en situación de crisis

es una falacia y sobre todo una falta de respeto a la propia justicia y a los usuarios de esa justicia lo que de verdad se esconde

es una crisis absoluta de capacidades para mejorar servicios públicos la administración de justicia efectivamente necesita mejorar y necesita mejorar el acceso a los ciudadanos necesita mejorar los tiempos de resolución

unas sentencias rápidas que resuelvan los problemas rápidamente necesitan mejorar en medios materiales necesitan mejorar medios personales

en definitiva mejorar su oferta mejorar la oferta y sin embargo lo que se hace

señorías los socialistas hemos presentado esta proposición no de ley porque no podemos consentir que el ministerio de justicia o de injusticia

lo que tantos años y tanto esfuerzo nos ha costado conseguir no no la subida no es solo

abusiva y con esta ley a la justicia le están birlando en sus propias narices y con su propia

como ven esa es fundamentalmente evitar esto es fundamentalmente la razón de esta proposición no de ley que como ustedes saben

grupo nacionalistas vascos y con upyd del siguiente tenor el parlamento vasco insta al gobierno de españa a adoptar urgentemente las medidas necesarias para excluir a las personas físicas como sujetos obligados al pago de las tasas judiciales y a garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial por considerar

llevada a cabo en la ley diez barra dos mil doce de veinte de noviembre así como la subida generalizada de su cuantía sin respetar el principio de proporcionalidad a la capacidad económica de las ciudadanas y ciudadanos obstaculiza y o impide en la práctica el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva segundo la presidencia del parlamento vasco dará traslado de este acuerdo al gobierno de españa así

desde el grupo socialista agradecemos la disposición para el acuerdo tanto por el grupo nacionalista vasco como por upyd y solicitamos
del resto de los grupos de la cámara el apoyo a esta transaccional gracias eskerrik asko

gracias presidenta hemos firmado una enmienda transaccional

con esta transaccional que hemos firmado y con

gallastegi lo cierto es que ya nosotros en el congreso de los diputados presentamos la correspondiente enmienda de totalidad a este proyecto y una serie de enmiendas parciales porque nos parecía un disparate uno de los mayores disparates que se han cometido

en este país lo cierto es que estamos hablando de una ley que recorta sin paliativos un servicio público esencial y que además intenta responsabilizar a los propios ciudadanos a los que se acusa de un supuesto exceso de litigiosidad

o incluso una enfermedad lo cierto es que esta ley es profundamente injusta que en modo alguno puede considerarse una mejora o incluso tampoco una variación del sistema de tasas actualmente vigente el que estaba vigente antes sino una completa modificación del mismo que va a suponer una merma evidente de derechos los ciudadanos a los que literalmente se les va a impedir en muchos casos el acceso a la justicia vulnerando de este modo el derecho a la tutela judicial efectiva contemplado en el artículo veinticuatro de la constitución española con el nuevo régimen se amplía el ámbito subjetivo de las tasas

que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita cuyo acceso

muy restrictivo la tasa que antes solo tenían obligación de pagar las empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios fuera superior a ocho millónes de euros ahora van a tener que ser abonadas no solo por todo tipo de empresas sino también por cualquier particular que se vea en la necesidad

sin tener en cuenta con carácter general su capacidad económica y eliminando incluso la exención a favor de las entidades sin ánimo de lucro que a partir de ahora

a las nuevas tasas tampoco cabe despreciar la posibilidad de que el novedoso establecimiento de las tasas jurisdiccionales a las personas físicas pueda conllevar efectivamente un aumento en las solicitudes de justicia gratuita provocando precisamente el efecto contrario

con esta medida que por otro lado es evidente es de naturaleza recaudatoria se amplía también el ámbito objetivo al extenderse la tasa

el orden penal lo cual podría provocar una indeseable huída hacia ese ámbito jurisdiccional en detrimento del civil o mercantil en aquellos casos que puedan reclamarse los correspondientes derechos en ambos órdenes al margen de lo anterior lo más grave viene dado por las elevadas cuantías

van a conseguir que sea imposible por antieconómico iniciar cualquier tipo de reclamación de importe reducido las cuales son por otra parte las que afectan a la generalidad de la ciudadanía fomentando también con ello la cultura del impago y del incumplimiento

y no ningún tipo de vicio oculto o querencia de la ciudadanía por meterse en pleitos si anteriores reformas de nuestro ordenamiento han sido

o eliminando trabas o costes lo cierto es que la presente reforma la presente ley va precisamente en la dirección contraria y por eso nos parece un absoluto

se pretende dotar a la reforma de cierta legitimidad constitucional con la cita en la exposición de motivos de la sentencia del tribunal constitucional veinte barra dos mil doce referida al anterior sistema de tasas pero tal

pues la misma cuestiona la misma sentencia cuestiona precisamente la eventual legalidad de este tributo

que la cuantía de las tasas establecidas son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso

en términos irrazonables que es lo que ocurre ahora

sentencia lo cierto es que el resultado de dicho ejercicio apunta precisamente a la inconstitucionalidad de la ley en resumen y por terminar se trata de un recorte de un servicio público esencial se trata de una ley profundamente regresiva

a los ciudadanos es una merma evidente de derechos para los ciudadanos es una medida de naturaleza exclusivamente recaudatoria ley que fomenta la cultura del impago y del incumplimiento y es una ley que obstaculiza claramente el acceso a los ciudadanos a la justicia y para terminar y en nuestra opinión

es una ley claramente inconstitucional y profundamente injusta de ahí la enmienda transaccional que hemos

la iniciativa que ahora debatimos generó ya polémica durante su tramitación y sigue alimentándola una vez aprobada seguramente lo segundo es consecuencia de lo primero

al importantísimo derecho que poseen los ciudadanos para pedir justicia

esta ley fue aprobada en el congreso en un acto en el que los diputados de todos grupos de la oposición se marcharon de sus escaños expresando de esta manera su enfado por el que consideraron el desprecio de los usos parlamentarios pero no es solo que se haya posicionado en contra todo el grupo de la oposición también como se ha dicho

colegios de abogados procuradores etcétera etcétera inclusive el propio consejo del poder judicial ya lo hizo en la fase de elaboración

si tal y como se señala en la exposición de motivos de esta ley de lo que se trata

del exceso de litigiosidad creemos que no se ha acertado con la medida

creemos que se debiera analizar en profundidad esta cuestión y seguramente coincidiremos

de reformarlo para aliviar este problema la cuestión es cómo y para reducir la litigiosidad hay que establecer entre otras cuestiones

reforzando procedimientos como la conciliación o la transacción pero de eso no se habla para nada en esta ley sin embargo se ataca este problema mediante el establecimiento de nuevas tasas y la subida desmesurada de otras al hacerlo de este modo con esta ley nuestro grupo entiende

la impresión de que existe una justicia a la que solo tienen acceso los ricos y poderosos con esta ley el servicio público de la justicia se encarece

por lo que con esta ley de tasas estaría pagando dos veces el servicio y eso nos parece un claro retroceso con esta ley como se ha dicho

algo aberrante en un estado de derecho habrá una parte importante de la sociedad que se verá excluida del acceso a la justicia en todas sus instancias provocando su indefensión

por ejemplo va a convertir en algo imposible sostener un pleito judicial contra las grandes empresas de servicios electricidad telefonía las cadenas comerciales los bancos o las compañías aseguradoras todos ellos con una ilimitada capacidad litigadora

no va a compensar presentar una reclamación en los juzgados en

por cuanto el coste de las tasas a pagar va a superar el coste de la reclamación a presentar de este modo la ley de tasas judiciales va a terminar expulsando de la vía judicial a los consumidores

va a provocar una disminución del consumo porque los comerciantes no van a facilitar a los compradores el pago aplazado de los bienes ante la posibilidad de impago de tales bienes

las infracciones leves la imposición de la cuantía de la multa es inferior

particularmente interesante que es el de el relativo al problema de las costas

las tasas deben abonar la parte que pierde el pleito aunque no haya sido ella precisamente la que haya presentado el recurso aesto es una cosa curiosae

porque no puede hacer frente a las tasas no se libre de tener que pagarlas señorías

recurrir y le dan razón digamos en la segunda instancia

no obstante el empresario puede recurrir la decisión y en ese caso

el trabajador está obligado a pagar las tasas pero esto no solamente puede ocurrir en los trabajadores contra las empresas sino también a las pequeñas empresas

y a nuestro juicio más grave todavía parece su aplicación

por ejemplo la protección del derecho a la intimidad de un menor por la vía civil para proteger la intimidad de un menor por la vía civil se puede llegar a pagar como mínimo y solo en tasas dos mil trescientos euros si hay un recurso al tribunal supremo

una demanda con estas previsiones no se está primando con ello a los infractores

y sus derechos y no se puede impedir o disuadir del acceso a la administración de justicia imponiendo unas tasas excesivas las cuantías de las tasas son excesivas y por ello impiden a muchos ciudadanos como digoc el acceso a la justicia en todas sus instancias

por todas estas razones nuestro grupo ha suscrito una enmienda con el grupo socialista y con el grupo upyd y

eskubide berdinak dituzten emakume eta gizonez egindako gizarte bat bermatzeko queremos a través de este debate visualizar la confrontación de dos modelos porque entendemos que hay

que pretende a través de sus medidas demoler el conjunto de libertades ciudadanas

en el que durante mucho tiempo se sustentó lo que se llamaban los regímenes democráticos

les quiere llevar a generar un nuevo proceso constituyente que deje sin derechos a los ciudadanos y ciudadanas sin derechos laborales sin derechos sociales sin derechos de ningún tipo y lo que es peor

un proceso de cambio político y social que nos acerque de verdad y nos garantice la igualdad la solidaridad

porque este debate es un debate que ataca en este momento al corazón de la tutela judicial efectiva y al derecho al acceso a la justicia

por parte de quienes me han precedido en esta tribuna pero también nos señala con rotundidad algo más evidente la democracia de la que tanto se habla en esta cámara de la que se ha hablado hace escasos momentos

pero no precisamente por quienes señalan los que se llenan la boca hablando de democracia está amenazada por quienes dirigen y rigen los designios del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas a través

están ejerciendo el rol de servidores de esas clases dirigentes que son las que asumen que la democracia es un obstáculo

sobre el resto de ciudadanos y ciudadanas y ese es el contexto en el que estamos por eso están haciendo lo que están haciendo en el terreno judicial y en todos los terrenos

de quienes vienen determinando como tienen que ser las cosas desde hace mucho tiempo y por eso están demoliendo como les señalaba con anterioridad los basamentos fundamentales de cualquier elemento democrático que dignifique la existencia de un estado eta ez gaude hemen neurri zehatz baten inguruan eztabaida izateko ez

por un sistema judicial elitista con beneficios para los que más tienen y con dificultades para los que menos tienen y por tanto menos capacidad para sostener un proceso judicial no es solo recaudatorio que también sino que también es disuasorio pretenden alejar

a aquellos que no cuenten con recursos ni con capacidades suficientes en definitiva quieren sacar de la posibilidad y de la voluntad de obtener justicia a la mayoría de la ciudadanía hay muchos antecedentes que avalan esa posición o esa apuesta por el sistema jurídico elitista que ustedes defienden su intento de reforma del consejo general del poder judicial

la ley de tasas que se ha mencionado con cuantías desproporcionadas que atentan contra la tutela judicial efectiva la privatización de la justicia la inexistencia de inversiones en justicia

con absoluta facilidad cuando uno ve la lentitud de procesos como el de bárcenas

y sobre todo también el endurecimiento del código penal devenidos de asuntos puntuales con impactos en la opinión pública pero que a la vez son absolutamente compatibles con indultos ofrecidos a la carta como a conductores temerarios o incluso con medidas de favor para conductores temerarios en otras latitudes como en cuba y en el caso del señor carromero

se ve con la carencia de propuestas claras ante desahucios y todo eso que he señalado yo a groso modo no lo dice eh bildu no son conclusiones que obtengamos nosotros porque consideremos que ustedes son nuestros antagonistas políticos todo esto lo señala todos los estamentos judiciales que antes les han señalado les han señalado jueces para la democracia

francisco de vitoria la asociación profesional de la magistraturatodos se han reunido todos para decir esto

y lo han hecho de manera uniforme y mire que es difícil juntar esas asociaciones

bihurtu da y cuales son las excusas y justificaciones que ustedes o que el partido popular

para llevar adelante este catálogo de reformas judiciales uno que quieren agilizar la justicia es absolutamente mentira porque si ustedes

de trámites judiciales que ustedes utilizan como argumento para implementar medidas como estas solo se sustanciaron en sentencias un millón seiscientos setenta y tres mil ciento veintisiete correspondiendo el resto

de numeraciones sobre un mismo trámite judicial por tanto no existe esa saturación que nos hace estar en la cola de europa como argumentan pero de otro lado lo argumentan o lo justifican hablando de la optimización de recursos para financiar la justicia gratuita y también es falso porque ustedes también olvidan y también lo dice el presidente del consejo general del poder judicial

se redujeron los gastos de la asistencia judicial gratuita en porcentajes que van desde el dos coma ocho por ciento hasta el tres coma seis por ciento no hay por tanto

ese gasto judicial y optimizarlo es proceder a suprimir la audiencia nacional y es desde luego dejar de financiar

renunció a la tutela judicial efectiva yo no sé si estamos militarizando el estado español

décadas en lo que tenía que ser un sistema democrático porque ahí sí podrían encontrar los recursos y las herramientas necesarias para conseguir que la justicia en el estado español fuera siquiera siquiera parecida a la de cualquier país democrático al que poder homologarse pero es evidente que no es eso lo que persiguen

que mujeres que son maltratadas por la violencia machista hacia ellas tengan que pagar trescientos euros para acudir a un tribunal a divorciarse

les decían antes que solo buscan favorecer a las grandes empresas o trasnacionales y es cierto

de reclamar frente a estas pudiendo tener que abonar por el paso de tres instancias judiciales más de diez mil euros

de usuarios y usuarias contra grandes empresas como por ejemplo y que casualidad o las entidades eléctricas atacan a los parados y paradas con el tasazo y por si fuera poco los hacen coincidir con una reforma del código penal que equipara el fraude a las prestaciones por desempleo

se llamen estos bárcenas correas o demás van a permitir ustedes señorías del partido popular que el delito cometido por cometer fraude o por incurrir en fraude en una prestación por desempleo sea punible

mientras que para los ladrones de cuello blanco van a permitir que solo sea considerado delito a partido de ciento veinte mil euros entiendo entendemos que el resto irá vía

errático como el que señalo por todo ello creemos más necesario que nunca tanto denunciar la inconstitucionalidad y carácter antidemocrático

de justicia español el señor gallardón y exigir la necesidad de contar con un sistema judicial propio

ágil cercano a nuestros conciudadanos y conciudadanas que es la base que tanto

justo e igualitario y esto es justo la antitesis de lo que hoy estamos soportando

un gran mérito han conseguido aunar en su contra a la inmensa mayoría de la ciudadanía tanto de euskal herria como también del estado español ustedes

y eso ya es meritorio ustedes han conseguido que lo que azorín un escritor dijo en mil novecientos tres dirigiéndose

absolutamente presente y real que las leyes se hacen para los ricos mila esker eskerrik asko matute jauna

mire que me sonaba el discurso que acababa de oír señor matute porque mire que lo he oído durante unos cuantos años en esta cámara referido

y de democracia si cuando usted estaba en izquierda unida sabe

no era el que se entiende en los países democráticos de europa sino que su concepto de democracia era otro ya sé que me lo reconoce

al hablar de derechos humanos que sabemos a qué democracia se refiere usted señora gallastegui nos ha presentado una proposición no de ley

solo hablamos de tasas por lo tanto vamos a hablar de tasas y no de la tutela efectiva vamos a hablar de tasas en su iniciativa nos dice que el señor felipe gonzález anuló las tasas judiciales lo cual es cierto y se le olvida decir que el gobierno del señor rodríguez zapatero con un preámbulo que decía que era

en la ley de veinticuatro de marzo de dos mil once extendió la tasa a los juicios civiles procesos monitorios

introdujo el depósito judicial para poder recurrir y ahora nos tendremos que hacer una pregunta después de estos discursos que hemos oído aquí

pero en justicia puede haber tasas resulta que ya había tasas antes del actual ministro había tasas por lo tanto parece que sí

que dijo que sí que podía haber tasas señor maneiro no solo el constitucional y el europeo

y luego veremos si me da tiempo a contestar a todos que es que en europa tienen tasas mucho más altas desde hace mucho tiempo para todo el mundo

que haya justicia gratuita no significa que la justicia sea gratis que es frase de ese tribunal constitucional

nos decía el señor matute que la justicia gratuita a disminuido el costo cada año

la señora gallastegui tendrá los del gobierno vasco y la señora mendia más

porque solo en dos mil once se disparó ya hasta doscientos sesenta y nueve millónes de euros más de cincuenta millónes respecto al año anterior yo no sé que datos maneja usted ni cómo los hace ahora vamos a ver por qué se hace una ley reforma de las tasas que ya existen

que lo pidieron los jueces otra cosa es en qué querían que se gaste la recaudación que lo pidieron los gobiernos autonómicos

básicamente los gobernados por el partido socialista y me estoy refiriendo a asturias me estoy refiriendo al gobierno vasco

del tripartito que pedían que se reforme y que haya que aprobar en el orden social la insuficiencia de ingresos

estos planteamientos venían de comunidades autónomas gobernadas por el partido socialista

también era demandada alguna reforma por los abogados que llevaban los turnos de oficio y estos mismos gobiernos no les pagaban ni en tiempo ni en plazo porque además no tenían dinero pese que el señor matute diga nos vengan ahora diciendo que cada vez se gastaba menos

y por último es evidente que hay que financiar la justicia gratuita no la financian los que tienen derecho a ella y aquí hay un principio que por lo visto cada vez que sale un tema a ustedes les parece

que es que paga la justicia el que la usa y que más tiene pero paga solo

una parte ínfima porque esta reforma que se está planteando en el mejor de los casos y si se recauda lo previsto no llega ni siquiera a costear el diez por ciento del gasto en justicia por lo tanto es una semitasa por decirlo de alguna forma

nos han venido aquí hacer un discurso demagógico todos ustedes pero para izquierda unida puede haber tasas

para ciu no solo puede haber sino que además ha puesto otra tasa en cataluña

también judicial partido socialista sí si lo ponen ellos o si lo piden ellos o como ellos lo piden para el pnv sí porque con las que había tampoco dijo nada

le parece bien hasta la de cataluña sí sí porque me he leído el debate

y una de las cosas que achacaba es a ver si estas nuevas tasas y va a ver duplicidad de cobro de tasas y que lo de la cataluña estaba ya muy bien me lo he leído y sé de lo que estoy hablando ya que se ha hablado de los jueces

francia que tiene el deposito judicial sesenta y seis millónes de habitantes seis coma cinco millónes de actuaciones un tercio menos ahora

porque en alemania las tasas suponen el cuarenta y cuatro por ciento del coste en portugal el cuarenta y uno y en españa si se llega que ya veremos

porque hay algunos colectivos que no están muy de acuerdo con la reforma porque la reforma que ha propuesto el gobierno del señor mariano rajoy es para financiar la justicia gratuita la justicia gratuita las comunidades autónomas y que evidentemente la comunidad autónoma que quiere recibir esos ingresos voluntariamente podrá hacerlo

el derecho a la tutela efectiva

a los ciudadanos que menos tienen a mí me hace mucha gracia su enmienda de transacción y luego se lo comentaré

yo no sé si ustedes se han leído la reforma se han leído algo o han venido aquí a contarnos su

las multinacionales y esto tal y estas cosas pero en fin los demás podían haberse

todos los de la justicia gratuita señor matute y todos los demás qué me están diciendo que los pobres no tienen derecho a acceso

y ustedes lo saben y los saben todos se va a incrementar la cuantía para poder acceder a la justicia gratuita por lo tanto quiénes van a estar exentos

incluye a las de violencia de género incluido separación y divorcio señor matute al maltrato infantil y a los discapacitados que hasta ahora no estaban incluidos dentro de la justicia gratuita

todos los juicios penales no hace tantos minutos la señora gallastegui estaba haciendo aquí una pregunta de si nos parecía bien que un conductor que hubiera bebido le saliera gratis el juicio y a ella parece que le parecía muy mal

claro a lo mejor no se está planteando que hay que poner tasas en materia penal

o a lo mejor hay que poner las tasas en función del delito que a cada uno le parece bien o no o en función de qué hay que poner las tasas en el sistema penal o en materia penal porque si empezamos a hacer demagogia aquí con cada amiguito de cada uno o lo que nos parece a nosotros cada uno bueno pues le digo

todos los de primera instancia social además están exentos en los recursos los autónomos todos los de capacidad afiliación menores protección de derechos fundamentales los monitores y verbales que no superen los dos mil euros

todos los administrativos cuando se acude por silencio administrativo o inactividad de la administración por supuesto

evidentemente alguien se quejaba ah a ver si va a tener que pagar costa con costa las tasas judiciales el que no ha pleiteado pues claro

pague las tasas sí porque ha obligado a eso porque no es obligatorio ir a los juzgados

si se quiere usar cuando se quiere usar y usted nos decía que de eso no se habla en esta ley sí sí se habla porque hay un sesenta por ciento de bonificación si la solución es extrajudicial o sea hay un veinte por ciento de bonificación si se cumplen los procesos

el sistema telemático pero si además se acude al arbitraje

se me ha terminado el tiempo así que en la siguiente intervención hablaré

de su enmienda y no sé por qué cuando en todos los debates que tenemos todo el mundo dice que los ricos tienen que pagar más y los pobres no no sé por qué aquí

de unas tasas que no permiten el acceso a los ciudadanos a la justicia estamos hablando de unas limitaciones a un derecho fundamental

casi total la posibilidad de que muchos ciudadanos de este país puedan acceder a los tribunales de justicia a exigir sus derechos es una cuestión meramente crematística es decir

con la cantidad de dinero que tiene que abonar previamente a la interposición de la demanda o a solicitar la tutela de un determinado juzgado simplemente

seguridad de conseguir una sentencia favorable y una sentencia que cumpla con las perspectivas

abonar esa cantidad de dinero previa al acceso a el ejercicio de un derecho fundamental esa es la cuestión

señor damborenea y usted lo sabe el tribunal constitucional lo dejó bien claro dijo que efectivamente las tasas eran constitucionales siempre y cuando limitaran el acceso de las personas a la tutela judicial efectiva que es lo que estamos discutiendo al acceso a los tribunales hablaba usted de justicia gratuita y la justicia gratuita se paga con las tasas mentira la justicia gratuita se paga con los impuestos también porque hay personas que tienen derecho a la justicia gratuita que pagan sus impuestos tendrán derecho a justicia gratuita porque cumplen con los requisitos de los beneficiarios establecidos por la norma que son

ganar menos del doble del salario mínimo interprofesional vigente o como se llame ahora

de bienes suntuarios en fin todas esas cosas que usted sabe y que yo no lo voy a decir

esos señores pagan la justicia gratuita con sus impuestos y no es precisamente

tiene que acceder a la justicia para exigir muchas veces sus derechos y lo que le corresponde que es en definitiva el fin de la justicia quien abusa además

el abuso está muy claro usted conoce exactamente igual que yo que la regulación española en materia de costas prevé esa cosa que se llama temeridad que no es otra cosa que traducida al esperanto es abuso del derecho

que todos ustedes tienen que conocer porque son ejemplos en fin son sangrantes hay veces que el hecho simplemente de una sentencia desestimatoria o una sentencia en flagrante error en la primera instancia

va a dejar sin posibilidad a muchos ciudadanos de que vayan a la segunda

que se resuelva de manera razonable un error judicial pero es que hay otras cosas que son absolutamente imposibles

de consentir por ejemplo sabrán ustedes

un problema con un sufrimiento fetal en un parto para reclamar una indemnización por unos daños

por ejemplo hoy aproximadamente once mil trescientos euros para una reclamación de trescientos euros por el nacimiento de un bebé

sí sí un tetrapléjico en accidente de tráfico un ocupante de un vehículo que va a la vía civil

y que tiene que reclamar por su tetraplejia pues tendría que pagar aproximadamente

gente joven por ejemploq pues tendría que pagar

y así sucesivamente de lo que se trata fundamentalmente y usted lo sabe como yoy y además

hay que defender lo que hay que defender muchas veces pero usted lo sabe exactamente igual que yo este tipo de situaciones no se pueden dar

es que uno para reclamar sus derechos no tiene capacidad económica que le permita ejercer ese derecho

cuando el mismo consejo general del poder judicial está diciendo que esta no es la vía no creo que haya que tener

en saco roto lo que los propios jueces el propio gobierno de los jueces
hablan en relación con este asunto eskerrik asko

no tenía previsto intervenir señor damborenea pero no me puedo resistir a lo que usted está diciendo por tres cuestiones en el asunto de ahí de arbitraje hay que recordarle que los acuerdos que se alcanzan

en fin estamos en el negocio de los árbitros en esa materia dos cuestiones más nos ha acusado aquí de que no leemos

hay un asunto el articulo ochenta y dos in fine señor damborenea no sé si lo conoce pero se lo recomiendo que lo lea y usted que es tan

la fiscalidad etcétera etcétera fíjese lo que dice en caso de que no acompañase el justificante de pago dice la falta de presentación del justificante de autoliquidación

a que se refiere el precepto dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento según proceda es decir aquí no actúa como en un caso

ejecutiva y actúe en consecuencia no aquí lo que se está diciendo es un auténtico destrozo en los derechos del litigante se le impide la posibilidad de continuar el procedimiento y por tanto en derecho sabemos que cuando se pierde el procedimiento por el tema de

el derecho muchas veces por tanto es una como decía antes

eso sí que es poner auténtico precio a la justicia es decir por un tema de una tasa se está

que referida que existen sentencias del tribunal superior de los derechos humanos sobre esa tasa y es cierto pero se refiere a la sentencia del caso

léaselo con detenimiento porque dice que

dice que si bien un sistema de tasas no es per se contrario al derecho de acceso a la justicia

y en particular a la capacidad económica del sujeto que pretende acceder a los tribunales

comentamos del pago de las tasas a los que tienen derecho a la justicia gratuita pero el tribunal europeo va más allá y obliga a

en cada caso finalmente señor damborenea qué le parece el siguiente caso que ocurre

que tiene unos ingresos de quince mil euros anuales y por tanto no es de aplicación

que quiere interponer una acción de responsabilidad por daños y perjuicios por importe de un millón doscientos mil euros sabe usted lo que tiene que pagar de tasas

cree usted que se facilita el acceso a la justicia a alguien que tiene que destinar el pago de las tasas judiciales el cuarenta por ciento de los ingresos brutos anuales

está usted de acuerdo con eso nosotros creemos que de facto eso sí que es
impedir el acceso a la justicia besterik ez eskerrik asko aldaiturriaga jaunak

voy a empezar con el señor damborenea y le voy a rogar que me disculpe porque voy a ser breve con él no es

aunque relativamente duro es de agradecer que le suene de discurso me señala que no he cambiado tanto

que se acentúe más un discurso que intenta señalar las desigualdades de sus políticas producen pero ya le digo que para eso tiempo tendremos y también le digo una cosa que seguramente ya sabemos desde este momento y sabíamos antes que mi concepto de democracia y el suyo homologables que para mí lo que ustedes hacen difiere mucho de lo que tiene que ser un sistema democrático eso es así de cierto y probablemente lo que hace muchos países europeos también por lo tanto tampoco

manejábamos le diré que entiendo que la ocupación y preocupación del partido popular en estos momentos más en días como hoy no pasa

con las que hoy ocupan los medios de comunicación pero si hubiera hecho la mínima consulta con su grupo parlamentario en el congreso de los diputados incluso con compañeros de bancada que tuvo en este hemiciclo

son las que el propio presidente del consejo general perdón el propio presidente del poder judicial trasladó

pero decía más usted hablaba también sobre

los antecedentes en torno a la existencia de tasas se ha olvidado uno que tiene relevancia por cuando tiene algún grado de parentesco con el actual ministro de justicia fue un diputado por zamora que se llamaba josé maría ruiz gallardón

quien señalaba que había que suprimir las tasas porque generaban desigualdades no lo dijo nadie de eh bildu

que parece que como dice el proverbio oriental deben de ser los únicos que miran al dedo mientras los demás miran a la luna lo he suavizado un poco porque tampoco se trata de ofender a nadie

nosotros nos vamos a abstener a la proposición o a la enmienda transaccional que se presenta por varias cuestiones la primera por que no se plantea el recurso de inconstitucionalidad

y aseverar sobre una historia que es cierta es decir somos el parlamento vasco y algo podemos hacer podemos presentar un recurso de inconstitucionalidad y parece que no queremos hacerlo porque no se incluye en la enmienda transaccional

sino que el anterior gobierno dijo que lo iba a hacer y no lo hizo el anterior gobierno compareció el día cinco de diciembre diciendo que la portavoz del equipo en funciones que aún dirige

no se ha hecho sin embargo se anunció a eso

no tiene ningún otro nombre porque no se ha hecho no se ha hecho no se ha hecho es tan sencillo como eso pueden ir dónde quieran lo hemos incluido nosotros porque queremos que se haga y entendemos o no entendemos del todo por qué no se ha podido incluir esa reflexión o esa petición en la enmienda transaccional no sabemos si incluir la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad potestad que se le otorga a este parlamento a través

no se pueda hacer porque pueda quebrar relaciones de confianza que se quieran trabar con el presidente del gobierno español ya décimos desde ahora no solo con este tema para todos

no lleva a ningún escenario de solución posible y positiva para este pueblo

del grado de igualdad en las relaciones y no creo que el señor rajoy esté por aceptar un grado de interlocución igualitaria entre su gobierno el gobierno del estado español y el gobierno que usted representa que es el gobierno de la comunidad autónoma vasca

con una cuestión señalaba el señor representante del partido popular señor damborenea que estábamos diciendo cosas que son absolutamente erráticas yo no soy quién para meterme en los llamados al orden que haya que hacer contra nadie de ningún partido pero hay un ciudadano que se llama miguel lorenzo que dice que está totalmente en contra de los importes porque en muchos casos se va a producir injusticias es concejal en a coruña del partido popular hay otro señor que se llama juan carlos castro que dice que esta ley es una barbaridad que cualquier elefante entraría en una cacharrería con más sigilo que gallardón en el ministerio de justicia

porque es como decir a la gente que no tiene derecho a que su caso se revise por un tribunal superior

es concejal del partido popular pero así un montón de testimonios y todos estos no están sacados de ninguna revista subversiva ni revolucionaria

que se llama abogados y que es la revista del consejo general de la abogacía como comprenderá poca veces manejo yo estos datos

de la enmienda que al final es lo que se va a votar porque nosotros estábamos de acuerdo

y que con las que se ponen para todos los españoles bastaba también estábamos de acuerdo con la que había presentado el partido nacionalista vasco que era que el gobierno de españa

pero al final entre todos ustedes han firmado una que dice lo siguiente

y luego nos dicen porque es que las tasas no respetan el principio de proporcionalidad y garantía y en relación con la capacidad económica

pues no deja de ser peculiar decir que todas las personas físicas quedan fuera incluido el mayor accionista del bbv

y a lo mejor el panadero que tiene una sociedad en la panadería que es con la que lo lleva ese sí tiene que pagar las tasas y dónde está su proporcionalidad

durante este último mes en todos estos plenos cuando se hablaba de que aquí cada uno tiene que pagar y da igual si es físico o jurídico en función de los ingresos que tiene ahora de repente no nos inventamos una nueva fórmula en este caso para la justicia la fórmula tiene que ser distinta por qué qué pasa que el partido popular en madrid les ha pasado por la izquierda y es el más progresista

a ver si resulta que estamos en ese debate y ese es el problema que tienen ustedes que a partir de ahora evidentemente el que más tiene va a pagar más y el que no tiene no va a pagar y el que menos tiene no va a pagar y además están exentos

han dicho nos decía la señora gallastegui que la justicia se paga con impuestos sí claro

no para el gobierno central del partido popular porque esta medida

todos querían las tasas todos querían las tasas pero cada uno para lo suyo

que eso es para financiar la justicia gratuita que pagan las comunidades autónomas por lo tanto

quieren porque no se les puede obligar a recoger el dinero para financiar la justicia gratuita y pagar a los abogados de una vez cuando corresponde podrán hacerlo

cero euros nos dice la señora gallastegui que si nos quedamos solos y no hacemos caso a nadie

pidieron que se pusieran las tasas incluidos gobiernos del partido socialista ahora hemos tenido un debate antes del decreto de justicia gratuita en el que en fin no creo que absolutamente nadie estaba de acuerdo con lo que aprobó el anterior gobierno vasco no se hizo caso

y ahí sí que tenían en contra absolutamente todos los colectivos señor

se hace vamos a ver yo no le voy a decir a usted que no pueda ser mejorable

una escala de ingresos por poner un ejemplo como

pero que esta ley de tasas va a eso a que el que más tiene paga más

y además se incrementan los que están gratis con el derecho a la justicia gratuita pues es evidente que afecta a mucha más gente a mucha más gente que antes y por lo tanto eso es lo que pretende esta ley

es que efectivamente se mejore todavía más en el trámite que falta cuando se apruebe definitivamente la reforma de la ley de la justicia gratuita

y señor matute me dice usted

muchos señores del partido popular que no les gustan muchas de las cosas que hace el partido popular en algunas incluso yo mismo lo cual

lo cual no quiere decir que sigan siendo del partido popular y apoyando a un gobierno que lo que está haciendo en este caso es

en beneficio de los ciudadanos que más necesidad tienen para poder acceder a la justicia gratuita que son los que tienen derecho a esa justicia gratuita y a incrementar los beneficiarios de esa justicia gratuita que esa es lo que subyace en esta reforma y que es lo que al parecer

intervengo para defensa de la proposición no de ley presentada por el grupo popular vasco y no está en mi ánimo

conciliar la vida laboral con la vida familiar o personal y por tanto además como este debate ya sea producido en esta cámara y fue una iniciativa con la que se cerro el último pleno de la legislatura anterior que fue la aprobación

empresa señorías no me voy a alargar pero sí quisiera

parlamentario popular como les decía esta ley se aprobó en el último pleno de la legislatura anterior y fue una de las propuestas que ha supuesto un gran empeño por parte de este grupo y que afortunadamente

una ley que regula y propone acciones concretas encaminadas

en el país vasco en el marco de nuestras competencias y que entre esas actuaciones se establece el mandato de elaborar un plan

e interinstitucional y ese es precisamente el contenido de nuestra propuesta

hemos considerado necesario la fijación de una fecha de entrega mi formación política está y ha estado siempre comprometida

los auténticos creadores de riqueza y de empleo y esto todo basado en dos principios un amplio reconocimiento social a la figura del empresario

esta iniciativa que se debate coincide en el tiempo precisamente con el anuncio por parte del gobierno de españa de una serie de propuestas dirigidas a fomentar el emprendimiento y muy especialmente entre los jóvenes colectivo que más está sufriendo las consecuencias de la crisis tal y como nos indican las estadísticas

nuestro compromiso el compromiso del partido popular en una serie de iniciativas como

en una serie de iniciativas medidas de apoyo al trabajo autónomo y a impulsar

apoyar a los que ya han emprendido para que puedan consolidar su proyecto y crear empleo y avanzar en la mejora de la potenciación social

que aquellos que han fracasado tengan una segunda oportunidad se pondrá en marcha para ello una estrategia de emprendimiento y empleo joven una de las medidas que yo creo que ha tenido un gran eco es el de la tarifa plana los cincuenta euros en los seis primeros meses de la cotización social porque apoyar el emprendimiento señorías es apoyar el crecimiento es apoyar en definitiva

de protección social los diferentes grupos han presentado enmiendas de totalidad a la propuesta del partido popular y hemos logrado llegar a una enmienda de transacción en la que

era el de establecer una fecha para que el gobierno tenga el compromiso de traer en un momento concreto ese plan de emprendedores finalmente hemos logrado llegar a un consenso y será

de sesiones en el que el gobierno tendrá que traer ese plan de apoyo a la actividad emprendedora de carácter interinstitucional

para su debate en este parlamento se ha añadido además la propuesta del partido socialista

esta iniciativa con el desarrollo de la ventanilla única a través del servicio vasco de emprendimiento señorías no quiero alargarme más puesto que esperemos que se instale también a lo largo de esta legislatura

en nuestras intervenciones espero que también el resto de los grupos parlamentarios sigan por este camino porque creo y quiero dar las gracias a los grupos parlamentarios por su disponibilidad para llegar al acuerdo fundamentalmente yo creo que donde estaba la exigencia que es el grupo nacionalista vasco que finalmente ha accedido a poner esa fecha

sesiones quiero agradecerles por tanto su disponibilidad y esperar que el gobierno vasco atienda la demanda hoy va a manifestar esta cámara legislativa agilice los trabajos para contar cuanto antes con este documento que permita una vez remitido a este parlamento
su debate por parte de todos los grupos parlamentarios muchísimas gracias eskerrik asko quiroga andrea zuzenketak aurkeztu dituzten

gracias presidenta lehendakari señorías es una satisfacción empezar esta legislatura desde el primer día reuniendo acuerdos y grandes consensos teniendo en cuenta que este parlamentario como quien dice ayer

con harta dificultad para lograr alguna convergencia o acuerdo

reproduce básicamente los elementos de nuestra enmienda de totalidad lo cual hace mayor mi gozo sin embargo más allá de proclamar esta autocomplacencia

permítame señora quiroga que discrepe porque es verdad que es el último punto y a todos nos entran urgencias de recién casado pero quiero decir que después de un letargo prolongado de este parlamento cuando entramos ya directamente al turrón creo que conviene dedicarle algún espacio de tiempo por eso me van a permitir que yo agote mi tiempo si puedo evitarlo lo evitaré pero

lapso pues apenas hemos podido entrar en materias en materias que son importantes como la que propone hoy el grupo popular

a esta sesión con el propósito de la enmienda de no empezar desde el primer día

por lo tanto ruego que las observaciones que vienen a continuación no las tomen como un reproche político sino en todo caso como un intento de aportación al debate de estas materias se ha dicho efectivamente que la iniciativa del grupo popular hunde

de la que fueron impulsores lo mismo que alguna otra iniciativa que veremos la semana que viene como la del

concretamente esta cuestión relativa al plan cuatrienal

en el artículo trece de la ley y nosotros creemos que no somos partidarios de diseccionar la ley de forma fragmentada y hacer de ella digamos un debate por entregas creemos

empaque debieran de tratarse de una forma también global monográfica y de forma exhaustiva no de forma como digo fragmentaria

en la enmienda cierta perentoriedad cierta inmediatez en el plazo de ejecución de este plan tiene que ver con el hecho de que dicho artículo trece

claro si se demora mucho si se demora mucho el gobierno en realizar este plan

y aunque no lo dice el texto de la ley cabe suponer que es un plan que hace un gobierno en su inicio cuando arranca porque no tendría sentido

de distinto o el mismo signo no tendría sentido y por eso nos parece importante apelar a la

pero en otro orden de cosas también porque estamos hablando de temas importantes en el día de hoy es decir el emprendimiento es otra actividad

también en la lucha contra el desempleo no solo por eso sino por otras muchas más cosas y sabiendo las circunstancias que concurren a día de hoy y las necesidades que hay pues hacen más importante todavía la diligencia y llevar a cabo este tipo de tareas

vincular la propuesta de ventanilla única con el servicio vasco de emprendimiento porque en la parte

hablan de la creación de un órgano si bien luego en la parte propiamente prepositiva no lo mencionan entonces nosotros también por este afán de ir aglutinando cosas proponemos que esa ventanilla única

legal de la ley se lleve a cabo a través del servicio vasco de emprendimiento que ya viene funcionando y viene funcionando además

está planteado para ordenar el tráfico de toda la actividad realizada a favor del emprendimiento

legislativa de esta cámara que tiene que tener sentido tiene que tener sentido y tiene que ser

y voy a ponerle además para tratar de explicarme voy a poner

artículos que tiene la ley por ejemplo el artículo siete habla de accesibilidad normativa a fin de garantizar el mejor acceso a las normas el gobierno vasco publicará textos consolidados bueno

que el gobierno vasco publique textos consolidados en el plazo de dos meses o de cinco o de seis otra índice de carga a través del instituto diseñará pues también podría ser otra iniciativa por lo tanto digo que eso yo creo que lo que

muy atomizado y que no concretaría las cosas y por ejemplo el artículo seis que habla del informe de impacto en la empresa dice

el gobierno vasco a través de sus servicios jurídicos realizará un informe de evaluación del impacto en la constitución puesta en marcha y funcionamiento de las empresas

con lo cual quiere decir que la ley tiene que tener sentido tiene que tener digamos

y no puede ser ignorada a la primera de cambio pero quiero decirles que todo esto lo digo sin ánimo de reproche lo digo con el único ánimo de tratar de darle al trabajo que hace esta cámara de darle un sentido y darle un tratamiento

en su globalidad por supuesto agradezco la disposición al acuerdo tanto del partido popular como del partido nacionalista y quiero expresar también

para el grupo nacionalista se ve a través de esa transacción que no todo lo que hicimos los socialistas en el gobierno estaba mal sino que ya se empieza a ver

y veremos que algunas de sus realizaciones en el futuro también se verá que tenían todo el sentido nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna

sin lanzar ningún reproche a la gente más a los

pero creo que hay que poner las cosas en su sitio y cuando el pse habla de autosatisfacción por lo menos me llama la atención que los seis meses que han

no hayan hecho nada cuando el pse nos decía que en cuatro meses teníamos que tener el plan de emprendimiento hecho

para que presentemos el plan de emprendimiento pues me llama la atención creo que no hay tal motivo para la autosatisfacción por parte del señor itxaso más cuando

ponerle planes al gobierno que pudiera venir cuando

dependiendo del mismo departamento pero dicho esto creo que

dos mil ocho desde que en europa empezamos a padecer una crisis importante de nuevo

distintas instituciones empiezan a

empujar el emprendimiento la señora quiroga nos ha hablado de medidas en españa

ella y yo cómo el nueve de enero se acaba de presentar también un plan por el consejo de europa en el que se intenta potenciar lo que

el gobierno vasco elaboró un plan de emprendimiento que lo dejó preparado para el gobierno que viniera

estuvimos hablando de la tramitación de esta ley

un plan decíamos que era más interesante disponer de un plan que no de una ley

era más ágil que podía responder a las necesidades del país de una manera más efectiva pero el partido popular y el partido socialista insistieron en la necesidad

con que las urgencias nos

ya tenían plan preparado sobre emprendimiento un plan

si se analiza cumple con casi todas las características que reclama la ley actual es un plan interdepartamental que intentaba

carencias que encontramos en este momento en el sistema vasco de emprendimiento

que dentro del plan de choque para la creación del empleo que

se va a incorporar el plan vasco de emprendimiento

es un plan necesario es un plan muy importante y que si en los años ochenta salimos de la crisis fue gracias a que se hizo una apuesta por el emprendimiento a que el gobierno vasco en aquel entonces fue capaz

de preparar herramientas para que los ciudadanos vasco toda su sociedad pudiera crear empresas crear cooperativas ya fuera la industria o ya fuera los servicios lo he dicho y creo

necesario insistir más en ello creemos en este plan es un plan que cuando abandonamos el gobierno vasco en el dos mil ocho

un plan que se volverá a trabajar ahora que se volverá a contrastar con todos los agentes implicado en el área de emprendimiento

que marca la ley y que espero dispongamos de él pronto
en este parlamento para que los distintos grupos podamos hacer nuestras aportaciones muchas gracias eskerrik asko etxeberria jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda

si también se están dando desahucios en lonjas hipotecadas para el desarrollo del inicio de una actividad empresarial si bien es cierto que no se puede generalizar y que no todo el emprendizaje de este

no y que incluso algunas de esas iniciativas que se han llevado a cabo por estas personas también pueden tener ciertos visos

por supuesto no podemos confundir el fomento impulso a la actividad emprendedora con querer fomentar el autoempleo

en situaciones desesperadas por otra parte debemos hablar también

desde la educación la mayor parte de la juventud vasca al finalizar sus estudios la mayoría el ochenta por ciento

como una salida profesional si entendemos que el emprendimiento es necesario

de empleo sino que también por la necesidad de innovación en tecnología industrial para revitalizar

de un nivel tecnológico medioybajo se ve necesario también generar ciertas aptitudes

y habilidades emprendedoras en las personas desde los centros educativos para que en cualquiera de los casos

y capacitadas para optar por todas las vías de empleabilidad con garantías

que es necesario otro modelo de desarrollo ajustado a las necesidades reales de euskal herria combinando la actuación de las empresas públicas y semipúblicas cooperativas y especialmente pymes junto con la economía social y solidaria al margen de la titularidad de las empresas deben ser responsables económicas social y medioambientalmente para garantizar así la sostenibilidad entendemos

deberán participar en el desarrollo del mismo además de la administración pública otros actores sociales los sindicatos las agencias de desarrollo las instituciones educativas

profesional etcétera son imprescindibles los actores sociales en este plan

sí en el menor plazo posible también pero no podemos olvidar que este debe ser dentro de un eficaz plan de choque para el empleo en el que se identifiquen las medidas concretas que llevará acabo este gobierno que genere empleo y por supuesto un plan que evite
que se siga destruyendo empleo eskerrik asko zulaika andrea

gracias señora presidenta muy brevemente desde el escaño si me permite

buscando quién tenía más culpa o menos culpa de por qué el plan no estaba desarrollado yo creo que lo importante de hoy

es que estamos todos de acuerdo en que es necesario este plan de emprendedores que además hemos logrado tener el compromiso del partido nacionalista vasco que apoya y sustenta al gobierno vasco de que sea este período de sesiones el que vea

de emprendedores tendremos tiempo para discutir sobre esas medidas que se nos planteen señor etxeberria

de ibarretxe y que nos van a rescatar un plan de ibarretxe he sentido un momento de miedo pero espero que sea simplemente que van a hacer un corta y pega si con esto van a traerlo más rápido bienvenido sea y ya lo actualizaremos entre todos los grupos parlamentarios en esta cámara lo importante es que cuando antes

que además luego tenga un reflejo presupuestario para que sea una realidad

un trabajo importante sé que es un plan interinstitucional y que eso supone poner de acuerdo a varias instituciones cada una

pero considero que en este momento se hace ese esfuerzo o sino no entiendo que otra prioridad puede tener el gobierno vasco que no sea otra
que buscar instrumentos y este lo puede ser que generen empleo en estos momentos muchísimas gracias eskerrik

con su permiso presidenta desde el escaño bueno en primer lugar decir que

he expresado precisamente esa voluntad y para intentar aclarar

así como la legislatura pasada era verdaderamente difícil para este parlamentario lograr reunir acuerdos

replica la enmienda de totalidad que hemos presentado el grupo socialista y esto es verdaderamente

luego decirle al señor etxeberria que el cómputo de tiempos que hace me ha parecido un poco

seis meses el gobierno socialista desde que se aprobó la ley que no había hecho nada claro la ley se aprobó el veintiocho de junio y el veintiocho de agosto el gobierno socialista convocó elecciones anticipadas

entonces claro en ese espacio de tiempo con un verano por medio decir que son seis meses sin hacer nada me parece

un tanto tendencioso pero de todas maneras tomaré en cuenta esta unidad de medida para futuras intervenciones gracias eskerrik asko itxaso jauna

las unidades de medida son las que son segundos minutos meses y son las que han transcurrido cuatro meses son lo que usted planteaba

desde que se aprobó la ley el gobierno socialista no hizo ningún paso en este sentido es más en los distintos debates les dijimos que tenían ustedes un plan

en lakua que lo podían utilizar impulsar y tampoco hicieron nada y a la señora quiroga no sé usted ha sentido un escalofrío al mentar cuando yo he mentado al lehendakari ibarretxe

una ley o cualquier cosa que sea aprobada por este parlamento no me creará ningún escalofrío ni cuando se mente nunca
y creo que el plan que a usted le ha creado un escalofrío fue aprobado por este parlamento muchas gracias eskerrik asko

zulaika andereak zurea da hitza sí a ver yo también siendo muy breve

a la señora quiroga comentarle que

no solamente hay empresarios que también hay mujeres empresarias a pesar de que no son tantas como nos gustarían

existen mujeres y luego bueno sí que nos parece muy importante vamos a apoyar la

que cuando se realice ese plan haya también medidas de seguimiento

que no ocurra lo que está ocurriendo ahora con muchas empresas a las que se han concedido importantes cantidades en ayudas bien para la adquisición de maquinaria de terrenos otro tipo de inversiones y bueno pues esas empresas se están deslocalizando están generando un montón

y se van con las manos y se dan de rositas que se fijen esas medidas de seguimiento y no solamente en ese sentido sino que cuando se conceden ayudas

hay otro tipo de ayudas que también se fijen unos objetivo

que igual en los planes hay que modificar porque para el fin que se habían pensado

que viene de españa que está negociado también con la patronal española patronal que

el paro juvenil con el salario mínimo
interprofesional para los jóvenes sin más besterik ez eskerrik asko